el parlamento vasco insta al gobierno vasco a realizar un estudio sobre los actuales marcos de competición tanto estatales

de los clubes de euskadi orientado al desarrollo del marco vasco de competición así mismo insta al gobierno vasco a que durante el dos mil catorce

el ámbito de competición de los clubes de euskadi orientado al ámbito vasco eta gainerako taldeei animatu

gracias señora presidenta buenas tardes lehendakari

pues brevemente bueno el acuerdo de la mayoría parlamentaria en relación con esta cuestión ya está el

la enmienda pero señora ubera

vasco el marco vasco de competición se desarrolla

todos los días esta proposición no de ley es una

innecesaria es un totum revolutum mezcla muchas cosas no dice nada al final el gobierno pues ha metido a hacer un plan dentro de un tiempo

pero en cualquier caso yo creo que el trabajo se hace se hace todos los días

y donde ya llevan trabajando mucho tiempo antes de que usted llegase a esta cámara en materia

el marco debe ser el más amplio posible por la calidad de la competición por la cualificación la formación de los deportistas la mayoría del deporte en el país vasco se desarrolla ya se desarrolla en el marco vasco de competición y también en otros marcos eso es lo bueno además el marco vasco de competición ya se está desarrollando ya se desarrolla pero lo bueno es que

se desarrollan y se mueven en otros marcos no solamente en el vasco en otros muchos marcos de competición esta proposición no de ley

es dar complicación a algo que no lo tiene quiere utilizar al deporte quiere utilizar a los deportistas una vez más nosotros no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en que se utilice al deporte y a los deportistas no nos gusta

las obsesiones políticas mucho menos con el deporte deporte significa ámbitos abiertos buscando el mejor nivel y eso se puede

de formas muy diversas y es que aquí tenemos ámbitos tenemos marcos

vasco tenemos ámbitos español tenemos ámbito europeo tenemos ámbito mundial eso ya existe señora ubera eso ya existe y eso ya se desarrolla normalmente por parte vuelvo a decir por parte de clubes por parte de federaciones por parte de deportistas individuales por parte de deportistas noveles de élite

hay están todos organizados por las federaciones por las instituciones con competencias deportivas qué se necesita cambiar pues no se necesita cambiar nada

coordinación la colaboración en todo caso la interrelación

las facetas y de todas las funciones también aspectos de financiación efectivamente

de reducción presupuestaria en temas que también afectan pues a las federaciones

pero está claro que el marco vasco de competición señora ubera ya existe y se desarrolla todos los días todos los fines de semana se desarrolla fundamentalmente

ustedes cómo les irrita a ustedes que hombres y mujeres deportistas

si al final son sus obsesiones en relación con lo que funciona bien con lo que triunfa con lo que engrandece a nuestro deporte y a nuestros deportistas al final es eso

todos esos recelos mire si hay problemas y disfunciones habrá que arreglarlos pero los marcos deportivos están ahí los marcos

funcionan la justificación que usted presenta una justificación extensa está llena de subjetividades está llena de recelos está llena

unas interpretaciones negativas sobre cosas que funcionan bien ustedes complican y distorsionan todo lo que tocan y en este caso también el deporte

de totalidad que quería instar al gobierno y al entramado federativo

a incrementar a coordinar el ámbito competitivo autonómico estatal internacional en la búsqueda de una constante mejora es algo obvio es algo que ya hacen

institucionales entendemos que lo hacen que lo tienen que hacer y hemos comprobado durante mucho tiempo que se hace

de transacción en cualquier caso bueno la mayoría está ahí las obsesiones nacionalistas hoy les toca el deporte y ahora supongo que la segunda intervención la apocalipsis
de bildu tendrá otra vez como estrategia el deporte muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

y crear a los ciudadanos en este caso a los parlamentarios vascos una preocupación que creo que no es una de las prioridades de la sociedad vasca pero en fin asistimos a este debate y por tanto diremos lo que los socialistas vascos opinamos en el fondo creemos que es un debate que aunque no se quiera decir es unir identidad

una vez más y eso que el grupo proponente de esta iniciativa llama marco vasco de competición se inserta dentro de una estrategia política de construcción de un modelo deportivo intrínsecamente vasco del deporte es cierto que el deporte contribuye a crear identidad para unos más que para otros

pero lo que nos preocupa de este modelo es que la creación de marcos competitivos propios

como un medio para reclamar adhesiones que fueran ajenas a los valores propios del deporte la práctica deportiva entendemos ha de ser asociada a la participación diversa

que es lo que entiendo que bildu propone en esta iniciativa y defendemos que el centro de la preocupación política deber estar precisamente y sobre todo fundamentalmente en el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas por supuesto también a través del deporte

independizar de dicha causa política un elemento de conformación integración social como es el deporte en todos los estados porque el deporte no es una materia que tenga un contenido monolítico o unívoco

a posicionarse a favor o en contra también del deporte en función de cómo uno lo sienta nos parece realmente preocupante

ninguna competencia en materia de deporte y sí en cambio su artículo ciento cuarenta y ocho punto uno punto diecinueve dispone que las comunidades autónomas puedan asumir competencia en materia de promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio en aplicación de dicha previsión constitucional todas las comunidades autónomas han asumido ya

competencias exclusivas en materia de promoción del deporte o de los deportes y esta asunción por las comunidades autónomas de competencias exclusivas en materia de deporte

por lo tanto entendemos que lo que ustedes piden ya está ya se está desarrollando y las comunidades autónomas están haciendo lo que entienden deben hacer sin embargo ha de tenerse en cuenta

se atribuye tanto al estado como a las comunidades autónomas además la proyección internacional del deporte

la intervención del estado en base a sus competencias exclusivas sobre la relaciones internacionales

que en este tipo de debates hay algo por debajo que no se atreven a decir claramente si se quiere hablar de un tema concreto de selecciones vascas concretas

pues díganlo traigan una proposición no de ley concreta que diga claramente lo que se opina y opinamos porque ustedes también tienen representación

que es allí donde está la ley estatal del deporte al igual que quienes apoyan la iniciativa que hoy ustedes traen entendemos que de todo ello se concluye que el deporte en ambas dimensiones como expresión cultural y en su proyección internacional

por lo tanto hay razones jurídicas para cuestionar la validez la legitimidad de la creación de un marco vasco del deporte

y que realmente nos sorprende que lo apoye el grupo nacionalista vasco que es quien al final tiene que desarrollar este marco vasco del deporte a través de ese estudio que parece que van a hacer

no está regulado el marco deportivo en la ley catorce barra noventa y ocho de once de junio del deporte del país vasco si ya está

la proposición no de ley que nos presentan ustedes hoy vuelve a abrir el debate de la necesidad de crear un sistema vasco esta vez por medio de un nuevo marco competitivo pero es que existe ya

autonómica y como le he dicho internacional la competición este nuevo marco que ustedes propugnan vendría a superponerse al existente en el que por cierto están definidas la ordenación organización calificación y autorización de las competiciones deportiva por parte de las instituciones correspondientes

no define tales atribuciones institucionales y puede suponer desprender a las diputaciones de su competencia en esta materia y puede que a los suyos les moleste bastante

un evidente componente de exclusión se erige verdaderamente en un sistema de referentes únicos para los y las deportistas vascos y vascas

al plano autonómico provincial y territorial porque todo no se puede no se puede pretender estar en un lado y luego participar también de todo

competir es precisamente lo contrario de limitar la acción deportiva a un marco territorial único creemos firmemente que la solución a una de las necesidades del deporte vasco

no pasa precisamente por cerrar las fronteras por crear un proteccionismo competitivo todo lo contrario creemos que elevar el nivel competitivo del deporte vasco

y fundamentalmente por proteger los planes de tecnificación de las federaciones deportivas orientados a conseguir un nivel óptimo de competición de nada sirve crear un nuevo marco de competición

pero huecos a los que nos tiene acostumbrados el grupo proponente en este tipo de temas

incidamos directamente en el problema de falta de apoyos de coordinación que padecen los agentes implicados y dejemos que los deportistas compitan en libertad al final el deporte

el valor añadido que ellos dan en este caso a esta comunidad autónoma debiera ser de todos y para todos y al final se trae una iniciativa aquí y nos encontramos

sin haber hablado por ejemplo con esta portavoz que les habla en este momento no sé si hubiéramos llegado a acuerdos o no

se hacen interpretaciones libres quizás puede que equivocadas aunque después de haber escuchado aquí su intervención

pero se llama cortesía parlamentaria al final hemos presentado enmiendas que yo creo que están en manos de todos el poder llegar a acuerdos o no

estamos de acuerdo que el gobierno vasco inicie un proyecto de cambio que busque la implicación de todos los agentes deportivos e instituciones

un proyecto que potencie y favorezca la progresión de las modalidades deportivas

la estructura organizativa de la competición actúa como un elemento vertebrador

en diferentes ámbitos el diseño de la estructura de las competiciones y su posterior aprobación corresponde a las federaciones deportivas de cada modalidad

a las diferentes federaciones y no a ningún estado badakigu denok

erantzuna daukagu non beste gauzaren artean honela esaten zuen en cuanto a las conclusiones aún no se está en disposición de remitir se prevé que está podrá estar disponible para finales del primer trimestre izan dezagun pazientzia eta

leyendo la amplia justificación nos quedaba una serie de dudas tanto en generalidades como

no hay una solución universal para todas las modalidades deportivas se debe asumir la singularidad de cada modalidad deportiva

ubera hablaba de que quería hacer pedagogía con esta iniciativa mire esta iniciativa son complejos no es pedagogía algo verdaderamente claro es que son complejos entender que la participación en competiciones deportivas estatales es caro incómodo obligado limitador de los deportistas y de sus aspiraciones

que la estructura deportiva española está obsoleta pues no es cierto no es cierto señora ubera eso le gustaría pero no es cierto no es así

y esos marcos de los que usted se refiere señora ubera ya están estudiados se desarrollan todos los días en este país afortunadamente se desarrollan todos los días

otros ámbitos de competición más importantes de ligas europeas en muchos deportes y ustedes vienen aquí ahora a seguir con el machaque de seguir deduciendo y además

el espacio de la actividad deportiva una vez más mire esto señora ubera para nosotros su planteamiento nunca en materia deportiva

sí gracias presidenta y muy brevemente al final señores de bildu siempre que pierden el debate con las ideas acaban descalificando a gobiernos anteriores

o antecedentes varios es lo que hacen siempre con todos los debates cuando pierden el debate de las ideas

se habla de este tipo de marcos vascos identidades vascas el argumento ese de que es que deportistas vascos tengan que hace el fin de semana no sé cuántos cientos de kilómetros con el dinero

quién son para hablar en nombre de la mayoría de los deportistas vascos es que yo creo y conozco por eso le voy a nombrar

me imagino que es lo que quería hacer yo le he escuchado señora ubera y lo que le pido respeto y que escuche porque hay diferentes opiniones

déjeme que gane las ideas por lo menos entonces

social de euskadi porque los deportistas vascos opinan

con una ideología que les ha votado otros a otra y otros a otra y la mayoría de los deportistas vascos no piden para la solución del deporte vasco un marco vasco del deporte

que hay que avanzar en el deporte vasco sí que hay que trabajar en la estructura del deporte vasco sí

pero con lo que ustedes proponen y con lo que ustedes van a votar se va a quedar todo igual porque una vez de que estos señores han salvado los papeles con ese estudio que usted les ha firmado qué qué les va a decir a los deportistas vascos cuando tengamos hecho ese gran diagnóstico

van a hacer desde lakua qué les van a ofrecer a los deportistas vascos acaso vamos a tener más deportistas de elite porque ese estudio esté hecho acaso esa no es la solución en euskadi uniendo siempre temas de deporte a temas de identidad no hacemos más que enredarnos en las tribunas

tenemos una carencia en el deporte real que no se soluciona con marcos vascos del deporte ustedes van a ganar el debate

en el segundo punto sí pero en el importante que es el primero que es el del diagnóstico gratis et amore

pues usted tendrá que decir a esos que dice que representan con esto qué y con esto qué con esto seguirán igual

y tan horrible ese diabólico estado de españa en el que por cierto quieren participar porque llevan a las elecciones cobran para pensiones para no sé qué para eso sí que interesa pertenecer al estado español

proponiendo la modificación de la ley del deporte en españa porque a raíz de ahí

pero no hagan brindis al sol que les encanta hacer para ese grupo de gente que parece que les escucha pero que no solucionan nada

quiere una modificación de ley propóngala quiere una selección vasca propóngala pero no mientan y no digan que la gente irse a jugar a valencia porque creo que el athletic juegue en valencia están encantados o la real encantados entonces no opinen por todo el mundo habrá unos que quieran y otros que no no se obliga a nadie de todas formas

un reducto de euskadi que en esto también tengamos un marco vasco del deporte marco vasco de decisión un marco vasco de la juventud y nos quedemos todos

eso sí cuando luego la gente como el otro día en el debate de la ley de juventud

entonces parece que españa tiene que opinar que el gobierno vasco tiene que opinar ahí sí

porque la gente sale fuera pues mire no aquí el criterio para todo

es también traer hacer del deporte un conflicto nacional o federal o llámelo como quiera porque no lo es y sobre todo creo que la sociedad tiene muchísimos problemas

y cuando se apruebe algo se firme algo por lo menos que sirva para algo porque este es un brindis al sol más que hacen en el tema del deporte el partido nacionalista vasco salva los muebles

y hoy gracias a esto ninguna medida concreta informes diagnósticos llenos que estarán las baldas de lakua llenas
para al final ninguna medida nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

estaba haciendo ya antes de firmar nosotros la transaccional se estaba haciendo ya

mesedez isiltasuna rojo andrea mire usted la respuesta que el día cuatro de febrero le dieron al partido

cultura como vulgarmente se dice lo mismo de lo mismo la misma retahíla de siempre

pero no lo hemos sacado nosotros lo han sacado ustedes lo que queremos es desarrollar el deporte en todos sus ámbitos en base a nuestras competencias en materia de deporte que nos ofrece el estatuto de autonomía del país vasco en su artículo diez

nadie ha hablado aquí de cerrar fronteras sino ustedes nosotros no hemos hablado de cerrar fronteras qué de malo tiene que el gobierno vasco busque alternativas

y optimización de los recursos y sobre todo que se ajusten a las necesidades y expectativas de los agentes deportivos de la comunidad autónoma del país vasco

de confrontación nosotros no estamos por la confrontación

y categorías que en vez de desplazarse en largos y penosos y caros

qué de malo tiene eso lo que se pide en esta transaccional

un estudio y un plan yo creo que son compatibles en definitiva lo que pedimos con nuestra transaccional es que se estudie y se busque optimización de recursos poder desarrollar nuestras competencias y compromiso

sí muchas gracias presidenta buenas tardes se trata de una proposición no de ley firmada con el partido popular para a través de ella

la constitución de una comisión especial de investigación sobre las ayudas las subvenciones y los créditos concedidos por las diferentes administraciones y organismos públicos a las empresas

e hiriko para en última instancia detectar y señalar las responsabilidades políticas que de esa investigación pudieran derivarse hablamos de sueños y hablamos de dispendio de dinero público con cargo a los impuestos

y hablamos de qué se puede hacer para aclarar estos asuntos y qué grupos parlamentarios van a votar a favor de esta iniciativa que tiene como objetivo precisamente ese las responsabilidades políticas habidas en estos despropósitos el sueño automovilístico del pnv tenía tres patas epsilon proyecto empresarial sustentado prácticamente de forma exclusiva en las ayudas públicas aportadas por el gobierno vasco

proyecto fracasado a día de hoy arakamendi una ciudad del motor que los nacionalistas querían construir en la llanada alavesa y que hoy no existe e hiriko una idea novedosa con capacidad de cambiar el paradigma de modalidad urbana en palabras de la actual consejera del gobierno vasco

otro proyecto fracasado el pasado doce de noviembre se produjo la primera sentencia judicial condenatoria contra los responsables del proyecto empresarial epsilon se trata ahora de localizar y señalar las responsabilidades políticas de este proyecto fracasado epsilon

de álava como un proyecto que tenía como objetivo fabricar vehículos de competición en los años siguientes este proyecto tuvo la capacidad y tuvo la habilidad sorprendente

terminaron superando los cuarenta millónes de euros este es un claro ejemplo de mala gestión de los recursos públicos que debe ser investigado poder concretar las responsabilidades políticas es por ello que se considera indispensable que se investigue todo el proceso la legalidad de las decisiones tomadas

la motivación de las decisiones tomadas las razones por las cuales se tomaron esas decisiones y finalmente los responsables políticos de todas esas

inapelable y evidente a día de hoy hay muchas preguntas que responder ni siquiera tendríamos tiempo material para explicarlas y exponerlas aquí todas ha habido iniciativas parlamentarias comparecencias tenemos cada uno de nosotros decenas y centenares de folios transcritos de las diferentes comparecencias habidas hay muchas preguntas

pero en todo caso creo que es evidente los fracasos que se han producido en relación a esos proyectos y es evidente también que por lo tanto hay unas responsabilidades políticas en determinados responsables políticos que decidieron en un momento determinado aportar

están fracasados por lo tanto hay una responsabilidad política evidente mala utilización del dinero público malas decisiones políticas

por qué el parque tecnológico de álava por ejemplo pacta una garantía de recompra en el caso de ejecución

cómo el parque pudo asumir unas potenciales obligaciones financieras a las que no podría responder por sus propios medios sin contar con el beneplácito de quien debería garantizarlas en el futuro es decir el gobierno vasco cómo es posible que el parque aceptará un planteamiento de desarrollo de negocio con una distribución de riesgo entre promotor e instituciones públicas estas últimas asumían la practica totalidad del riesgo siendo la aportación del promotor privado prácticamente simbólica en fin ya digo son infinidad

es obvio que todo proyecto empresarial tiene sus riesgos que necesitan tiempo que no ganan desde el primer día o que no son rentables en el corto plazo esto es una cosa y otra cosa evidente es que sean un saco sin fondo o que la proporción entre subvenciones crédito y avales de carácter público con respeto a la inversión privada desproporcionada en todo caso es un caso que evidencia la necesidad de controlar más y mejor el uso y el destino de los dineros públicos de saber a dónde van los dineros

por qué se destinan a determinados proyectos y no a otros para qué por qué y quién se beneficia en última instancia de ello

como para que haya sido valorado tan positivamente durante tanto tiempo por responsables políticos

de muchos años hablamos de un proyecto que fue presentado por el gobierno vasco como un proyecto estratégico el motor que impulsaría el desarrollo en euskadi y que incluso llevaría el nombre de euskadi por todo el mundo hoy no es nada

es muy desproporcionada el total de las ayudas públicas

supera los cuarenta millónes de euros más de la mitad de las subvenciones se las arrancó digamos el partido nacionalista vasco al gobierno socialista en distintas

prácticamente nula entre quienes refrendaron aquel famoso y sospechoso aval figuran cargos del partido nacionalista vasco entre ellos el ex presidente de los parques mauri lazkano la diputada foral alavesa arantza zenarruzabeitia el anterior responsable de minaño julián sánchez alegría

van más allá de estas personas y por lo tanto habrá que decidir y habrá que ver exactamente dónde se situaron o dónde están esas responsabilidades políticas lo cierto es que hace dos años y medio el proyecto entra en procedimiento concursal podemos decir también que por cada puesto de trabajo creado

en ayudas públicas en dos mil doce el gobierno vasco tuvo que asumir el pago de más de dieciséis millónes de euros al ejecutar kutxabank el aval por el crédito que epsilon no había pagado el administrador concursal saca a la venta el edificio por veinte coma cinco millónes de euros y en fin en dos mil trece se juzga al señor villadelprat que se le condena a varios años de inhabilitación

por agravar la insolvencia al retrasar su entrada en concurso y por salida fraudulenta de bienes en fin insistían

hace aproximadamente un mes la ex consejera ana aguirre y la actual consejera señora tapia insistían en que el proyecto fue apoyado por todas las instituciones por muchas instituciones que había varios partidos políticos que apoyaron este proyecto y que era un buen proyecto pero hoy es un proyecto fracasado incluso llegaron a plantear en esa última comparecencia

al parecer algunos pretendían seguir dando subvenciones de manera indefinida sin poder recibir a cambio de ellas nada es decir producción

o puestos de trabajo parece ser que estaban dispuestos a seguir dando subvenciones de manera

en fin hace solo unos días el gobierno de españa ha reclamado los diecisiete millónes de euros concedidos al proyecto estrechamente ligado a este caso

empresarial pero lo que es más importante de fracaso en la gestión del dinero por parte de las instituciones públicas se añade el proyecto hiriko y ciertamente es un proyecto es un proyecto empresarial que debe analizarse conjuntamente con el caso epsilon habida cuenta de las conexiones industriales económicas y políticas entre ambas

empresariales el proyecto de coche eléctrico asentó igualmente su actividad en un extraordinario desembolso de dinero público la firma

que venían del gobierno de españa y también por parte del departamento

lo promovieron dos colectivos por un lado la asociación para el fomento de actividades industriales y deportivas de automoción y un supuesto centro de innovación localizado

durante años se desarrolló el proyecto y se inició la construcción de prototipos y se realizaron diversas

e incluso se llevaron a cabo negociaciones para vender las primeras unidades para desarrollar el proyecto ya digo que las promotoras recibieron importantes subvenciones

los promotores presentaron en junio de dos mil trece un ere de extinción para toda la plantilla lo que supuso cerrar completamente un proyecto en el que se han invertido decenas de millónes de euros podemos dar algunos datos en relación a este asunto

el señor jesús echave uno de los representantes del partido nacionalista vasco en el anterior consejo de administración de kutxabank secretario de asociación el señor antia ex concejal del pnv en vitoria estrecho colaborador de otros pro hombres del partido nacionalista o quien es uno de los responsables de denokinn un ex viceconsejero del gobierno vasco hiriko absorbió millónes de euros de dinero público gran parte de los cuales el partido nacionalista vasco sacó

a cambio de apoyar distintos presupuestos generales que públicamente no tenía empacho en calificar previa y posteriormente como

al parecer le compensaba si era a cambio de alcanzar distintos objetivos entre otros financiación para este proyecto posteriormente fracasado lo que la actual consejera denominaba como idea novedosa con capacidad de cambiar el paradigma

está hoy en vía muerta este coche a diferencia de los presupuestos aprobados por el partido nacionalista vasco nunca será una realidad y mientras tanto

de esas cantidades de dinero público destinadas por distintas instituciones y aportadas por los ciudadanos vascos

de afypaida uno de los representantes del partido nacionalista vasco en el anterior consejo de administración de kutxabank

por alquilar a hiriko unas dependencias de su propiedad la firma gastó en sueldos en dos mil diez un total

euros la firma solo tenía en nómina a una persona afypaida prestó tres millónes de euros a una empresa ajena al proyecto pero de los mismos propietarios

etcétera y podemos dar nombres si ustedes quieren de empresas relacionadas en este tipo de acuerdos

en relación a esta cuestión se nos vendió un proyecto que generaría empleo y que sería positivo para el conjunto de la sociedad y lo que tenemos es un enorme

con personas de determinado partido político involucradas y con determinados dirigentes políticos y representantes institucionales como protagonistas de decisiones

y en todo caso absolutamente fracasadas más allá de que pueda haber habido ilegalidades o no lo cierto y lo evidente es que ha habido decisiones políticas claramente equivocadas y nosotros somos partidarios de que los representantes políticos que se equivocan

alarmante y provocan un costo tan evidente al conjunto de la sociedad se les señale y se les localice para conocer la verdad y para que se pueda saber qué es lo que había detrás

decisiones tomadas decía la señora tapia que de los objetivos que se plantean inicialmente a donde nos encontramos en este momento

y en eso estamos todos de acuerdo y efectivamente y entendemos que los responsables deben asumir por ello sus responsabilidades sus costosos errores hiriko también recibió generosas subvenciones del gobierno de españa y subvenciones generosas del gobierno vasco

ustedes tienen la decisión de si finalmente se constituye una comisión de investigación para conocer la verdad de lo que ha ocurrido nosotros evidentemente no tenemos fuerza suficiente para sacar adelante esta iniciativa ni nosotros ni los votos del partido popular sumarían los votos suficientes

de investigación pensamos que es indispensable y es de libro la puesta en marcha de esta comisión de investigación voy a decir más

corrupción política ligada a la utilización de las instituciones y del dinero de los ciudadanos para beneficio propio y de los partidarios y amigos

básicamente por esto es indispensable en nuestra opinión la puesta en marcha de esta comisión de investigación gracias y gracias al partido popular

gracias señora presidenta señorías señor lehendakari miembros del gobierno de nuevo buenas tardes

esta propuesta está presentada conjuntamente por nuestro grupo y el grupo mixto upyd el señor maneiro ya se ha referido hace unos segundos a la justificación de la misma

no va a incidir en ello nosotros consideramos necesaria esa comisión de investigación parlamentaria

que consideramos graves en la subvención las ayudas públicas los avales las decisiones orientadas hacia empresas hacia empresarios

notables fracasos empresariales alguien igual

quizá para descalificar esta iniciativa que queremos juicios paralelos pero desde el grupo al que representa eso no es así los juicios de verdad ya se están produciendo y ya hemos visto las consecuencias que han tenido en relación con lo que se

en lo relativo a la andadura de empresas como ha sido concretamente

y este fallo supone reconocer que dicho proyecto incurrió en notables irregularidades y que se sustentaba prácticamente de forma exclusiva en ayudas públicas aportadas por el gobierno vasco por otros gobiernos

controlar saber lo que desde el gobierno vasco y desde sus instancias pudo suceder por eso la proposición no de ley que hemos presentado en relación con que

acuerde constituir una comisión especial de investigación sobre las ayudas las subvenciones los créditos concedidos por las diferentes administraciones y organismos públicos a las empresas epsilon hiriko y a las responsabilidades políticas

también una vez más vuelvo a decir ya los ha explicado el señor maneiro

pero creemos que hay un importante grado de interrelación y afectan a un mismo fondo con orígenes y circunstancias a veces comunes en alguna de sus vertientes tenemos que recordar también que el propio gobierno vasco ha reconocido durante los días pasados las semanas pasadas que el fracaso de esa empresa se debió desde luego

y en ese sentido es como una petición de una comisión de investigación parlamentaria de las de libro

la forma de otorgamiento de subvenciones de ayudas de avales de créditos y qué organismos públicos participaron en las mismas y los por qués

además una vez de que en relación con estas comisiones de investigación ya se han subsanado ya se han superado algunas limitaciones o algunos defectos

transparentes con muchas menos dificultades que

hasta ahora y entendemos que eso será una buena función de transparencia también y de análisis desde este parlamento en relación con lo que ha sido dineros públicos y hay una cuestión que quizás sea después del análisis que podemos hacer de las decisiones

que se tomaron que sea la de las recomendaciones a veces lo más importante que puede haber lo más interesante que puede haber después del análisis de una

son las recomendaciones el hecho de qué se puede hacer después de identificar algunas disfunciones y algunos problemas recomendaciones que recogen y que deben recoger y que recogerían en su caso las necesidades de mejorar determinadas formas de hacer

eso ha pasado en las distintas comisiones de investigación que han habido en este parlamento vasco independientemente del grado de debate o de posición política que hubiese en relación con la cuestión de fondo

la noticia o siempre ha habido la cuestión de que ha habido recomendaciones y capacidad de pedir al gobierno que identificara que rectificara determinadas conductas y desde luego

también puede suceder así y nosotros el planteamiento a la vez de investigación el constructivo que debemos hacer es de identificar esos problemas

señores parlamentarios estamos hablando de varios millónes de euros atribuidos a proyectos empresariales fallidos y queremos saber queremos saber de la toma de decisiones de las justificaciones de los criterios queremos analizarlos para que estos no se vuelvan a repetir

como la secretaría técnica del consejo vasco de promoción económica

que han participado en la concesión de esas ayudas públicas o en la verificación en la autorización en el visado o en el asesoramiento o

y es objetivo y eso yo creo que debe ser analizado por este organismo de control el máximo que tiene este país que es el parlamento estamos ante una materia que hay que estudiar es bueno

no sucedan de nuevo en el ámbito de la competencia que nosotros podemos controlar que es el ámbito este parlamento controla que es el gobierno vasco y las sociedades públicas que de él dependen
y en ese sentido es el planteamiento que hacemos en relación con esta comisión de investigación y solicitamos a los grupos parlamentario que voten a favor de la misma muchas gracias eskerrik asko

de la proposición no de ley presentada por el partido popular y upyd porque creemos también que es necesario

nos preocupa y nos gustaría que los grupos proponentes nos aclaren la razón de la tardanza en el debate a esta iniciativa en noviembre el tema estaba claro y parecía que era necesario avanzar en esa comisión de investigación hoy estamos a finales de febrero cuatro meses han pasado ya y muchas comisiones con este asunto

le dé tiempo a realizar el informe sobre epsilon y a empezar el de hiriko o ustedes tienen otras motivaciones

el tiempo transcurrido ha dejado evidentemente sin virtualidad política nuestra enmienda ya que pedíamos seis meses desde la aprobación de nuestra enmienda a la totalidad y nos llevaría por ello muy lejos nos llevaría a dentro de otros seis meses más

si nos pudiesen aclarar ese punto se lo agradeceríamos ya que demostraría que realmente la enmienda que proponíamos

el debate que tenemos pendiente es el modelo que utilizamos desde las instituciones públicas a la hora de priorizar un modelo subvencionador en lo tecnológico pero sin retorno social alguno

o si por el contrario vamos a apostar por un nuevo modelo que realmente realice un análisis exhaustivo de los proyectos a subvencionar sobre varias bases por un lado la política estratégica de país por otro cuál es el modelo industrial que estamos impulsando

y por supuesto también si realmente lo que se está subvencionando o ayudando financieramente es a proyectos tecnológicos viables o no

ya que parecería que en muchos casos el dinero público sale demasiado fácil por las puertas y ventanas de la administración pública sobre todo dependiendo de quién solicita la ayuda

esas son nuestras inquietudes y también son las razones por las que queremos abrir no solo esta comisión de investigación sino también y en el seno de la misma las razones que anteriormente les he nombrado

no es aceptable ni admisible que se hayan dado ayudas millónarias sin control sobre dichos proyectos

hiciese un seguimiento no es admisible que se fuese a negociar a madrid una mayor financiación sobre estos proyectos y no sobre proyectos viables a nivel económico esto es exactamente de lo que estamos hablando y tal y como dije una vez también desde este atril vigilaremos muy mucho

y seguiremos atentos todos los pasos que se están dando para la venta de dichos proyectos

euskal herria bildu seguirá muy de cerca a aquellas personas que se encuentran detrás de ambos proyectos y que han utilizado ese dinero público para enriquecerse y es que

hay que ser consecuentes y por lo menos ningún grupo debería paralizar esta iniciativa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna

no me va a tocar recordar un poco el tránsito de este asunto porque los sucesivos intervinientes han ido relatando alguno de los hechos

porque después de muchas comparecencias en los últimos tres años en este parlamento yo creo que hay algunas cosas que ya empiezan a estar claras

en los que fundamentalmente empresarios privados han gestionado mal el dinero público y eso se ha visto en las sucesivas comparecencias también se ha visto

se concedieron ayudas y subvenciones a estos dos proyectos más desde el voluntarismo de construir

que a partir de un análisis de riesgo riguroso lo que sin duda supuso también una mala gestión de fondos públicos en cualquier caso hiriko

se lanza un proyecto sin apoyos en el sector de la automoción en el que se quiere incardinar en el que se quiere desarrollar además

como las homologaciones del producto y sobre todo se sostuvo únicamente con financiación pública lo que no es admisible en un proyecto privado en cuanto a epsilon

en una sentencia judicial de concurso culpable para su administrador único

también ha sido un ejemplo de mala gestión del dinero público como se ha visto ya en las comparaciones del mes pasado un asunto que ha surgido

intervenciones anteriores que es la cesión del rango hipotecario en la compra del solar y del edificio por el parque tecnológico de álava para

pero de lo que no cabe duda en cualquier caso es que los fondos públicos

la pasada legislatura el gobierno socialista llevó el caso epsilon a los tribunales que es donde se sustancian de manera fehaciente estos asuntos con el resultado

mercantil uno de vitoria que ha fallado como culpable el concurso de la empresa y ha condenado a su responsable el señor villadelprat

y a una inhabilitación de tres años para administrar bienes

culpable de haber agravado la situación de insolvencia al asumir nuevas deudas sin expectativa de poder atenderlas y considera además que este señor provocó

al vender la rama dedicada a la competición automovilística

precisamente por esto está abierta otra investigación penal en la que la fiscalía de álava ha denunciado

y a otro exresponsable de epsilon el británico por un delito de alzamiento de bienes en el caso de hiriko también es muy llamativo el uso de los fondos en cuanto a algunos sueldos elevadísimos

anteriormente todo ello ha hecho también que la fiscalía abra una investigación

porque hay indicios de que los propietarios han hecho un mal uso de parte de los fondos recibidos por lo tanto es en los tribunales donde está resolviéndose la responsabilidad del mal uso de estos fondos públicos en cuanto al tratamiento parlamentario de estas dos empresas la pasada legislatura mi grupo el grupo socialista

ezker batua aralar y eusko alkartasuna pidió nueve comparecencias nueve

el grupo socialista ha solicitado las comparecencias de la consejera de industria y del director que en aquella época gobernaba en el departamento

a fin de que explicaran las circunstancias motivos y condiciones en las que decidieron sus actuaciones para ello el grupo socialista pidió incluso habilitar el mes de enero como así se ha hecho creemos que es un procedimiento que da luz en estos asuntos por otra parte

que le ha pedido el parlamento vasco sobre este asunto cuando acaben las actuaciones judiciales y esté el informe del tribunal vasco de cuentas públicas

más completa y fehaciente por eso creemos que difícilmente podrá aportar más luz la comisión de investigación al menos

de cuentas sobre todo si tenemos en cuenta que volverán a comparecer la mayoría de las personas que ya han comparecido en algunos casos más de una vez respecto a estos asuntos en cualquier caso

el principio de prudencia y de rigor en la inversión del dinero público tanto cuando haya abundancia de fondos

las épocas de bonanza no pueden servir para relajar la atención sobre el destino de los fondos públicos

considerar que no está relacionado con una comisión de investigación me refiero a la revisión del procedimiento por el que se concede y se sigue el uso privado de las subvenciones públicas en algunas sesiones de este parlamento se lo he pedido directamente a la consejera

porque estoy convencido de que a la luz de la experiencia la revisión de ese procedimiento podría evitar el mal uso de esos fondos y además inducir una mayor eficacia

en una época de escasez con poca dedicación de fondos a este sistema

y necesitamos reformar el sistema para afinar las concesiones y sobre todo para controlar adecuadamente

a bildu el voto que le va a dar o va hacer como la señora rosa díez reprocharles por la necesidad que tiene

en navarra de bildu para poder abrir una investigación y una moción de censura tiene réplica cojamos

hasta la caída de lehman brothers más o menos momento en que se derrumbó todo el mundo que habíamos construido

y del bienestar público participarán o no de aquel posible bienestar pero la sociedad a bloque avanzaba por aquel camino allá estábamos todos como íbamos diciendo

y transpongámoslo a hoy y nos echaremos las manos a la cabeza por su dimensión

los gastos a los que me he referido son de hace diez o menos años y todos nosotros de una manera más o menos cooperativa

animamos a realizarlo estábamos allí la pregunta es por qué una desmemoria tan acelerada tan profunda ante hechos recientes

de las cuales alguno entre los que probablemente yo me encuentro las padezcamos pero estaño parece que todos los que me han antecedido las tenga la respuesta a tanta desmemoria se la voy a dar

no el cambio climático sino un interés político y donde estaba seco hacer llover

actos y actores se confundan y el espectador el ciudadano o el elector

las decisiones y el contesto que se han tomado gaur berrikuntzaz dihardugu

han preguntado y han sido respondidos pero no si no solicitan una comisión de investigación parece que poco hemos conseguido miren el proyecto epsilon recibió del gobierno vasco y gobierno central exclusivamente ayudas competitivas

digo que fueron tras exhaustivas evaluaciones técnicas y contrastadas con otras solicitudes de pronto el gobierno central no cumplió el segundo año del compromiso adquirido con el proyecto del parquetazo que no olvidemos que era una ayuda del ochenta y cinco por ciento y le recuerdo lo dicho en comisión

protestó por escrito a la ministra la crisis se nos había caído encima de golpe y este como tantos otros proyectos pasaron apuros serios

podrán sacar trozos de mail del gabinete asesor del parque tecnológico podrán aducir el informe del director de la oficina de control económico

y en la comisión mantenida en este parlamento ha dictaminado que resultó legal y conforme a la normativa eso sí se sorprende que se pida una investigación

pedido por esta misma cámara también sorprendería y mucho que al menos en la famosa operación de enero de dos mil nueve de las hipotecas

de hecho en el informe del tribunal escrito y entregado en esta cámara sobre sociedades públicas del dos mil nueve se da por buena y legal la famosísima operación

que si al organismo fiscalizador se le pide que haga lo suyo una vez que lo haga qué tenemos que investigar si el tribunal vasco

quedaría en su caso depurar las responsabilidades oportunas o ir al fiscal y para eso no hace falta comisiones no importa la fiscalización

mezclar en un totum revolutum las gestiones empresariales con gestiones de dar dinero público el resto da lo mismo hiriko ere ikertzea eskatzen duzue

responsable de cómo gestiona el gobierno vasco los millónes del hospital de eibar es el pp responsable de la gestión que haga de su subvención bihotz bizi a que no pues el pnv tampoco de la gestión de hiriko se está viendo fraude y malgasto donde había riesgo

autorizada por la ue que puede llegar al cien por ciento lo que por cierto no es para nada extraño y ustedes desde el gobierno socialista

la investigación se enfrenta a lo desconocido si no simplemente no sería investigación

investigar es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo o el propio einstein si supiese qué es lo que estoy haciendo

el resultado no ha sido la nada hay instalaciones maquinaria

cuatro patentes de valor en hiriko de valor real hay empresas interesadas en su compra y hay ciertas posibilidades de que el trabajo realizado fructifique demos tiempo esperemos si cualquiera de los dos proyectos hubiera triunfado del todo lo cual podría haber sido

estaríamos hoy discutiendo en este parlamento quién se pone por delante en la foto muchas gracias eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz

sí gracias algunas cuestiones que han planteado algunos de los portavoces decía el señor barrio que

gestionar bien el dinero público y quien gestione mal el dinero público que dé cuentas a la ciudadanía esa es la recomendación creo que en este caso concreto es importante saber qué decisiones se tomaron y por qué quién estaba detrás

a quién creo que este es el objetivo fundamental de esta comisión retraso en la presentación de la iniciativa señor lópez de munain no hay nada detrás

y la imposibilidad de incluir el asunto en los distintos órdenes del día se nos acumulan en algún caso distintas mociones o proposiciones no de ley además el mes de enero fue

a que pudieran comparecer la consejera y otra serie de personas en el mes de enero para tener más información y para que ningún grupo tuviera ninguna excusa de no votar a favor de esta iniciativa decía el señor vicente reyes que algunas cosas están muy claras comparto esto y decía también que lo que está claro es que los fondos públicos se han dilapidado ha habido fondos públicos

donde se esta resolviendo el mal uso del dinero público yo creo que no

las ilegalidades cometidas responsabilidades penales aquí estamos hablando de responsabilidades políticas

y gobiernos que se han equivocado mucho durante mucho tiempo y eso merece un juicio político aparte de cuando lleguen las elecciones evidentemente la ciudadanía decidirá eso es otro juicio político pero además de ese el juicio político de sentarnos en una comisión de investigación

conocer la verdad de los hechos por lo tanto responsabilidades políticas porque ha habido una serie de proyectos empresariales que han fracasado por lo tanto si fracasan hay una serie de responsables

no estaríamos hablando de esto evidentemente ustedes o algunos otros se estarían poniendo medallas pero es que no ha sido un éxito han sido un fracaso y por lo tanto hay que analizar

esto es una proposición no de ley una más de upyd

y cada grupo político es libre para apoyarla o no

en fin tenemos datos recopilados y nombres de empresas y de responsables políticos algunos los he dado tenemos muchos más tenemos una pila de información que ustedes también tienen no quiero insistir en ello pero es que hay tanta cantidad de dudas

hay tantas cosas que aclarar que como efectivamente ha dicho el señor barrio la comisión de investigación es sencillamente de libro hay tanto dinero

que la comisión de investigación es de libro hablamos de proyectos utópicos de castillos en el aire de proyectos fracasados de millónes de euros de dinero público que han sido dilapidados por lo tanto más allá habido ilegalidades o no en nuestra opinión esto merece un análisis político para determinar las responsabilidades políticas nosotros lo tenemos

señores del partido nacionalista vasco ustedes plantean trabas trabas y más trabas para evitar saber la verdad para que la ciudadanía no pueda saber la verdad para impedir que ustedes tengan que asumir sus responsabilidades para tapar

objetivo tapar sus chanchullos respondan por lo que ha ocurrido aquí respondan por lo que ha ocurrido aquí efectivamente como decía por lo tanto

es un juicio político hay que determinar las responsabilidades políticas en nuestra opinión no basta con las comparecencias habidas

no basta con toda esa información que todos nosotros tenemos delante con lo que ya sabemos cada uno de nosotros hace falta en nuestra opinión una comisión de investigación que ponga orden a todo eso y que seamos capaces de trasladar a la ciudadanía la verdad de los hechos ocurridos

señor tellería de hacer memoria no se trata de embarrar sino de aclarar de limpiar de clarificar no se trata de enredar absolutamente nada

o quieren taparla si quieren saber la verdad o mejor dicho si quieren que los ciudadanos sepan la verdad apoyen esta comisión de investigación
señores del partido nacionalista vasco a qué tienen miedo eskerrik asko maneiro jauna

ya le ha dicho el señor maneiro por qué tan tarde por la inercia

se presentó cuando se presentó y luego no pudo ser tramitado en pleno en aquel diciembre por la espera de las comparecencias y ahora pues estamos en febrero

iniciativa lo importante es que se ha tramitado y que hay fundamentos

ninguna otra cuestión rara que usted tenga que sospechar de algo y mucho menos con interferir como usted ha dejado caer labores del tribunal vasco de cuentas eso no es nuestro estilo señor lópez de munain el señor reyes ha mantenido una aptitud

parlamentaria que ha mantenido en comisión y con alguna aptitud también parlamentaria que se mantuvo en la legislatura pasada de exigencia

de reservas o de no sé por qué será pero bueno en cualquier caso es

y nosotros estamos convencidos de que acertamos nosotros con esta iniciativa

primer argumento de las decisiones que se tomaron en un momento determinado

incontroladas en el tiempo pero esta señor tellería ha salido demasiado mal epsilon e hiriko han recibido dinero público para proyectos empresariales fallidos

y ejemplos puede haber otros como usted ha dejado caer

demasiadas vertientes institucionales muchas decisiones mal tomadas y eso ha perjudicado a la sociedad

que justificar su rechazo pero yo creo que los ciudadanos saben que estamos aquí para controlar las decisiones que se toman de cómo se aplican los dineros públicos ustedes

es posible que en algún punto dramaticen

tragedia lo que es una función normal de un parlamento en relación con lo que pasa con los dineros dados a los particulares o con las decisiones que se justifican y con esos dineros que luego se convierten en proyectos

señor tellería los ciudadanos que han seguido por los medios de comunicación estas cuestiones que se refieren

quien liderará y traerá el cambio político sin duda será euskal herria bildu al igual que quien posibilitará la comisión de investigación hoy aquí será euskal herria bildu y los veintiuno parlamentarios y parlamentarias que votarán a favor de la misma

la crisis no puede dar explicaciones para todo no puede justificar absolutamente todo y lo que no puede llegar a justificar son las dejaciones en el control del dinero público o que un dinero público se haya invertido sin una razón aparente ya que

la aportación social de dichas inversiones parece que son muy bajas

muy caro ha salido crear esos empleos mientras que otros que se podían haber mantenido durante ese tiempo ni tan siquiera se han intentado con lo cual no todo es sobrevenido

sin una viabilidad posterior a nivel comercial pueden ser

con dinero público y que luego ese control sobre ese dinero público haya desaparecido

seguimos esperando dicho informe y seguiremos esperando el que tenga que hacer no solo para epsilon sino también para hiriko

que sería bueno que ese informe esté en el mismo tiempo o cuando se vaya a iniciar esa comisión de investigación más que nada para poder hablar de algo en concreto

y sin ningún tipo de solución o no aportará nada nuevo a lo que ya se ha venido a decir sin embargo dichos informes uno

a los y las responsables y ayudarán sobre todo en la labor de control que debemos

desde los partidos políticos o grupos políticos al final de lo que estamos hablando y yo creo que es lo más importante

tiene que trabajar un informe propio y tiene que hacer una serie de valoraciones políticas de lo que ha sucedido en estos dos proyectos pero también tenemos que hacer una reflexión

subvencionando y cómo lo estamos subvencionando y el control político existente y público existente sobre el dinero que se ha aportado esa es la reflexión que debería salir de fondo

en definitiva queremos votar un informe hecho en esa comisión de investigación

se verifique las responsabilidades políticas que existen y que evidentemente nosotros y nosotras creemos que sí que existen besterik ez eskerrik asko

imprescindible claro no solo estamos de acuerdo sino que hemos tirado de ello los socialistas en los últimos tres años en este asunto como he comentado con lo cual

penal sino como responsabilidad de las administraciones el tribunal vasco de cuentas públicas también

de un criterio técnico es decir estamos en un momento en el que durante tres años

a los tribunales o los trabajos impulsados por él a los tribunales estos casos y

muy clara muy completa de lo que ha ocurrido con esos fondos y es verdad porque lo han dicho los tribunales que han habido una serie de señores que se han aprovechado de esos fondos y no solo estoy de acuerdo

hay que revisar el sistema de concesión análisis seguimiento de los fondos públicos lo cual está bien pero señor barrio dice usted

que lleva haciendo durante tres años este asunto quizá no le interese escucharlo pero yo le voy a explicar le voy a replicar a lo que ha dicho es decir

el cambio de opinión es difícil cuando se tienen hechos de solicitudes constantes de comparecencias de

desde el punto de vista del control de los fondos públicos no puede decir lo mismo el grupo popular cuando se solicitó el

nueve comparecencias nueve para este asunto en este parlamento la comisión convocó en un solo día a tres y las otras seis quedaron en barbecho el presidente de la comisión era el señor sémper

el que tenía que convocar y al que se le dijo que convocara por favor un año entero un año

sin convocar de dos mil once a dos mil doce cuando había un interés evidente por solicitud por solicitud de que eso tuviera lugar

o por qué ahora mismo cuando se han sustanciado comisiones cuando se han dado explicaciones y los tribunales

no sé por qué ahora tiene que atacar al grupo tiene que atacar al grupo que impulsó precisamente

de esos fondos públicos malversados efectivamente por dos empresas

la única diferencia entre toda esta trayectoria durante tres años de análisis de interpelaciones a distintos miembros del gobierno mediante comparecencias pedidas por el grupo socialista y actuaciones del gobierno socialista esta comisión de investigación es yo ya digo todo lo que sea control de los fondos públicos está bien luego no nos vamos a oponer

en fin con una alegría enorme tampoco a una comisión de investigación en la que creemos que se ha analizado en profundidad cara a cara como se puede hacer en este parlamento con responsables de los distintos gobiernos el asunto ya está y que además

dirá al final lo que tenga que decir y los procesos judiciales o bien en marcha o bien en fase de investigación previa por la policía judicial dirán también lo que tengan que decir y redondearán el asunto pero oponernos aún así al análisis

se abstendrá ha tirado del carro se ha hecho numerosas comparecencias como digo e investigación de los fondos públicos impulsadas por nosotros y al final creemos que en fin

que unas instituciones analicen las responsabilidades también de las administraciones públicas de momento que un poco de tranquilidad pero no nos vamos a oponer

usted lo ha dicho señor maneiro y no ha sido el subconsciente y lo ha dicho consciente juicio político

no ha puesto en duda que haya ilegalidad lo ha contrapuesto un poco la legalidad es objetividad el juicio político es subjetividad y no nos da miedo

el juicio político el juego de mayorías y minorías los intereses son los que pervierten la objetividad y lo convierten en subjetividad en intereses eso es lo que me preocupa no me da miedo me preocupa porque también es verdad

todos los que han seguido por los periódicos la noticia quieren la comisión yo preguntaría cuántos ciudadanos han seguido por los periódicos

o una verdad porque estamos

juzgando con la perspectiva de hoy lo que ocurrió ayer y ayer hacía sol y hoy truena no resultaba extraordinario eran proyectos ambiciosos pero no fantasiosos

que nos podría poner en primera línea había una apuesta estratégica eso es verdad se trataba de proyectos que trabajados desde diferentes ámbitos pondrían a álava y a euskadi en primera línea de un sector

a desarrollar burbujas inmobiliarias se trataba de impulsar

mientras en euskadi pensábamos en aquello en castilla la mancha estaban haciendo un aeropuerto en ciudad real o en castellón un aeropuerto que sigue vacío bueno como el de foronda pero eso es otra cosa que ya han debatido esta mañana

mientras en derredor ocurrían cosas como que cuando el coste que tenía un palacio de música en gasteiz era de ciento cincuenta y cuatro millónes en dos mil nueve

cambia la línea política del ayuntamiento y aparte de lo que se había gastado se gastaron dos millónes

dinero público para no hacer obra pública la no incineradora de gipuzkoa ha costado trece millónes setecientos mil euros dinero público

en el caso de hiriko y epsilon se ha gastado dinero público para investigar e innovar para avanzar y no lo duden algo se ha avanzado datos y resultados hay

que un buen experimento lleva a muchos fallos pero a mucho aprendizaje

si a la hora de preparar este asunto y mirar toda la documentación veo

si veo a diputados generales alcaldes parlamentarios y ministros populares apoyando a hiriko cuando todo el mundo

pues mire más que una comisión de investigación que no me interesa s me apetece una comisión de cotillear cotillear por qué

para finalizar les voy a recordar lo que ante una propuesta bastante reciente de constitución de una comisión de investigación dijeron en esta cámara por ejemplo el señor unzalu del partido socialista votaremos no

porque les interesa que esta cuestión se alargue toda la legislatura a ser posible para que puedan seguir alimentando sospechas sobre la actuación del departamento de interior el anterior en manos del partido socialista en este caso es lo mismo pero del anterior del anterior el pnv o la señora llanos del partido popular

vamos a votar en contra de una iniciativa que a nuestro juicio no persigue el fin que usted ha dicho aquí no lo persigue

lejos de contribuir iba a entorpecer ese objetivo y por eso nosotros

que usted aquí pretende hacer y yo me quedo con lo que hizo mi compañero de grupo parlamentario y hombre brillante iñigo iturrate

la actuación de la comisión parlamentaria necesariamente se vería comprometida por el juego de mayorías y minorías el interés partidario y los prejuicios de los grupos políticos y de eso tenemos buena prueba en este parlamento en fechas no tan lejanas

aparece en el dictamen de una comisión de investigación sin haber sido citada a lo largo de toda la investigación ni aparecer en ninguno de los procedimientos a lo largo de esos meses

en el ámbito europeo las enfermedades conocidas como de baja prevalencia son aquellas que afectan a menos de cinco de cada diez mil habitantes

de los países de nuestro entorno pero los datos epidemiológicos

integratu baterako debemos continuar impulsando medidas de diagnóstico precoz como la incorporación de nuevas detecciones de enfermedades

para un diagnóstico rápido y dotando a los servicios de urgencia y a los servicios de atención primaria de información sobre enfermedades raras y sus centros de referencia

manteniendo la implicación de las instituciones en el desarrollo del plan de actuación de enfermedades raras y la garantía sobre necesidades asistenciales

su agradecimiento a las autoridades belgas en general y las de amberes en particular por el esfuerzo que vienen desarrollando para aclarar lo sucedido y encontrar al joven desaparecido

y redoblen la cooperación con europol y las policías de los países limítrofes y del resto de europa para investigar todas las pistas que aparezcan sobre el caso su solicitud al reino de bélgica y al resto de los estados miembros para que efectúen

por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos y el apoyo y la protección de las víctimas de delitos

un adecuado seguimiento de los procesos penales de acuerdo con los derechos de traducción información y asistencia que establece dicha normativa proposatzen du

asimismo recientemente una delegación de la comisión de derechos humanos del parlamento vasco pudo comprobar de primera mano cuál es la situación actual de la población saharaui

erreferendum baten bidez nazio batuen ebazpenen arabera tres insta a las autoridades marroquíes a que cesen las persecuciones

y a que liberen los presos políticos saharauis cuatro

en españa como único y legítimo representante del pueblo saharaui así reconocido por la onu bost espainiako estatuari eskatzen dio har dezala